gracias presidenta bien para que quede claro desde el principio por si no lo estaba los socialistas somos firmes partidarios del concierto y del cupo

del pacto estatutario y está amparado en la propia constitución porque ha sido y es un instrumento útil para mejorar la calidad de vida de vascos y vascas

perfectamente compatible con la colaboración solidaria con el resto de españa y esta posición de los socialistas vascos es compartida por el conjunto del partido socialista obrero español como se recoge en el documento de granada explícitamente

fijada en el programa electoral para las elecciones generales del próximo veinte de diciembre dicho esto los socialistas no queremos que el debate sobre el concierto económico y el cupo se quede en el estado en el que se ha planteado en las últimas semanas

la desinformación y el juego de intereses propio de momentos preelectorales por el contrario hemos echado en falta argumentos datos y altura política a la hora de defender y explicar lo que es y lo que supone ese instrumento singular de nuestro autogobierno porque no protege al concierto el que hace aspavientos y grandes declaraciones retóricas ni intenta convertir por puro interés electoral

o la actualización del cupo en una campaña organizada contra el concierto o un ataque al autogobierno en toda regla no se responde al desatino

pero ya que el debate está sobre la mesa y no se puede soslayar mi grupo pretende al menos que la discusión se encauce de forma constructiva útil y racional ese es el ánimo con el que presentamos la interpelación que defendimos el pasado día dieciséis y ese es el espíritu con el que traemos hoy esta moción

y quiero felicitarme porque hayamos sido capaces de alcanzar una enmienda de transacción que espero que sea capaz de recoger los apoyos de la inmensa mayoría

los socialistas vascos proponemos que esta cámara que ostenta la máxima representación política del país vasco reitere formalmente su compromiso con el concierto económico como instrumento que regula las relaciones tributarias entre el estado y el país vasco tal y como establece el estatuto de gernika y ampara la constitución española como un marco de relación singular pactado

coordinación y colaboración con el estado en materia tributaria y contribución al sostenimiento de las cargas generales no asumidas por la comunidad autónoma

asimismo pedimos al gobierno vasco y a la administración central que de acuerdo con esos principios se esfuercen en alcanzar un acuerdo para la actualización del cupo porque en nada ayuda a la comprensión de este mecanismo de que dispone euskadi el hecho de que estén sin liquidar los cupos anuales desde el año dos mil siete con diferencias económicas que alcanzan ya los mil doscientos millónes de euros

de la comunidad autónoma o la circunstancia de que por ese mismo motivo ni siquiera se haya empezado a trabajar en la renovación del cupo dos mil once dos mil dieciséis

en ese quinquenio un periodo por si alguien no se ha dado cuenta que termina el próximo año finalmente queremos instar a los gobiernos central y vasco a que se esfuercen en explicar en todas las instancias las peculiaridades de nuestro sistema de financiación para contribuir a que se conozca mejor y despejar prejuicios y valoraciones

pensamos que esa puede ser la mejor aportación que podemos hacer para preservar al concierto de opiniones desenfocadas y resolver los problemas reales que existen sobre la actualización del cupo

si no a todos sí a la inmensa mayoría política y social representada aquí en este parlamento los socialistas vascos no creemos que la estrategia más adecuada para conseguir esos objetivos sea la utilizada por alguna formación y algunas instituciones que no quiero señalar que consiste en dolerse ostentosamente de heridas no recibidas

de un instrumento de autogobierno que es de toda la sociedad vasca y precisamente por eso porque el concierto es de todos no puede ser enajenado como bandera particular de nadie lo dijimos en el anterior debate y volvemos a insistir la mejor forma de defender el concierto y el cupo es con más trabajo con más consenso y con más pedagogía

lo que piensa la ciudadanía de euskadi sobre diversos temas en otoño del dos mil diez se preguntó a la gente sobre el grado de información que tenía del concierto económico

que no había oído hablar del concierto esa fue la respuesta mayoritaria el cuarenta y dos por ciento dijo que sí había oído hablar de él pero no lo conocía bien y solo el nueve por ciento afirmó conocerlo bien aunque eso habría que contrastarlo básicamente es el mismo resultado que obtuvo en otro sociómetro realizado antes en el dos mil uno

la encuesta el resultado no variaría sustancialmente en otras palabras si los ciudadanos del país vasco manifiestan esa falta de conocimiento

no podemos sorprendernos de las opiniones equivocadas que se han vertido últimamente y que algunos han querido presentar como una campaña organizada a nosotros nos parece que sería mucho más provechoso encauzar los esfuerzos que se gastan en declaraciones retóricas

en la defensa en un trabajo sistemático de explicación del concierto y del cupo de su funcionamiento de la autonomía que concede en el ingreso y en el gasto y del riesgo

que va mucho más allá de la cantidad que pueda pagarse en concepto de cupo y que en poco o nada va a resolver los problemas estructurales de financiación de otras comunidades autónomas para despejar esos prejuicios e ideas erróneas hace falta también

algo que probablemente ha faltado a la hora de negociar el cupo ya sabemos que su cálculo no es sencillo pero el cupo no puede convertirse en un arcano oscuro y misterioso

y que solo aflora de vez en cuando en forma de una especie de cifra mágica que algo sea complejo

del mismo modo que la singularidad no está reñida con la transparencia y debemos reconocer que el establecimiento de las leyes quinquenales del cupo y la liquidación de los cupos anuales

muy dependientes de las circunstancias y urgencias políticas de los gobiernos de turno ese es señorías el ánimo que inspira al grupo socialista y con el que hemos venido a este debate a la hora de tratar de conseguir y afortunadamente así ha sido un consenso con los demás grupos que evite tanto el inmovilismo como el victimismo

en igualdad en cohesión social y en progreso de los ciudadanos no para avanzar casillas en procesos que algunos llaman de construcción nacional y precisamente por eso consideramos que la mejor defensa que podemos hacer del sistema de concierto es que las instituciones competentes se esfuercen de verdad

las divergencias enquistadas en la fijación de las aportaciones que corresponden a esta comunidad y al mismo tiempo y nos parece muy importante explicar bien a la ciudadanía en el seno de euskadi en primer lugar y en el resto de españa en qué consisten y qué significan desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político tanto el concierto
como el cupo muchas gracias eskerrik asko pastor jauna maneiro jauna zurea da hitza

muchas gracias presidenta buenos días a todas y a todos

debate debería servir para decir la verdad este es un debate

la verdad a la ciudadanía que creo que es la mejor forma de defender nuestro trabajo y de defender la política

y tantas patrañas que han comenzado ya a decirse en este debate

lo que nosotros queremos hacer es decir la verdad a la gente

el sistema de concierto económico está recogido en la constitución española pero desde luego no es compatible con la contribución solidaria con el resto de españa

ha planteado en su intervención desde siempre no solo

se han alzado voces contrarias a este sistema con los dos principales argumentos siguientes en primer lugar se trata de un sistema excepcional que únicamente se aplica en dos de las diecisiete comunidades autónomas españolas y en segundo lugar

es un sistema muy poco transparente y además su cálculo está sesgado a la baja provocando por ello desigualdad ciudadana y privilegios para unos ciudadanos

durante las últimas semanas efectivamente distintas voces se han alzado para criticar este sistema o el cálculo del cupo el propio secretario general del partido socialista

el líder de los socialistas catalanes miquel iceta el presidente socialista de la generalitat valenciana

la vicepresidenta y portavoz de la generalitat valenciana mónica oltra de compromís entre otros muchos

dejando caer o diciendo abiertamente que este sistema y el modo en que está calculado el cupo supone una sobrefinanciación para los ciudadanos vascos y navarros respecto a los

del partido popular de la comunidad de madrid ignacio gonzález y su entonces consejero de hacienda

que ninguna comunidad autónoma debe estar excluida de la solidaridad

también hace un par de años el líder de los socialistas catalanes señaló literalmente que si queremos una financiación justa empecemos por eliminar de la constitución española los privilegios que hoy existen otros dirigentes políticos e instituciones españoles durante los últimos años

cosas parecidas en el pasado reciente y en el pasado lejano quejas semejantes fueron planteadas por otras comunidades autónomas por tanto es un sistema cada vez más cuestionado porque efectivamente al final la verdad siempre

por activa y por pasiva un buen cúmulo de mentiras en relación a este asunto por lo tanto es un sistema cada vez más cuestionado de imposible defensa

upyd el único partido político que lo critica abiertamente en euskadi y siendo un servidor ciertamente como se me recordará posiblemente luego el único parlamentario vasco que lo pone en cuestión cuando hemos pedido en euskadi su revisión o directamente su supresión siempre nos hemos quedado solos cierto

en no pocas ocasiones en que hemos defendido con los mismos argumentos su revisión o directamente su supresión fuera de euskadi otros partidos nos han apoyado por poner un ejemplo durante la pasada legislatura en la asamblea de madrid

instar al gobierno de la comunidad a defender un nuevo sistema de financiación autonómica

en el que los ciudadanos del país vasco y navarra contribuyan a la solidaridad nacional y al sostenimiento del estado como el resto de los españoles y el partido popular apoyó la propuesta de upyd cuando iniciativas semejantes hemos presentado en otras instituciones

el resultado ha sido parecido la verdad como digo sale es decir las declaraciones de determinados dirigentes nacionales así como el resultado que han cosechado estas iniciativas de upyd en otros lugares fuera de euskadi

y la incoherencia del partido popular y del partido socialista obrero español

el mismo discurso siempre y en todos los lugares ya en dos mil cinco aguirre miembro entonces del comité nacional del partido socialista de euskadi con motivo del veinticinco aniversario del concierto económico escribía un artículo en el que afirmaba que los socialistas vascos tenemos la oportunidad de impulsar una

y que nuestra aportación al estado no respeta a los principios de igualdad progresividad y solidaridad establecidos por la constitución española y que los socialistas vascos decía escribía tenemos que preguntarnos si queremos ejercer realmente el socialismo siguiendolos principios según los cuales se fundó el partido político antiguo del país vasco ahí están además los artículos y los estudios realizados por distintos intelectuales economistas y técnicos independientes que saben del asunto ahí están las reflexiones realizadas por mikel buesa por carlos monasterio por ángel de la fuente por javier tajadura por joseba arregi que fue consejero nacionalista del gobierno vasco por josé maría ruiz soroa por francesc de carreras o por el propio

del partido socialista para la reforma de la constitución española que no hace demasiado definía el sistema de concierto como un sistema privilegiado de obtención

y otros muchos han venido planteando las mismas ideas aunque desde luego es cierto que solo ha mantenido un discurso diáfano en relación a esta cuestión y solo upyd ha defendido estas ideas en el parlamento vasco rompiendo de esa forma años de pensamiento único y haciéndolo no para conseguir votos sino para defender la igualdad la solidaridad y el progresismo estos son nuestros principios y lo vamos a seguir defendiendo en este sentido

comprensible que partidos políticos nacionalistas o partidos políticos conservadores defiendan este anacronismo que blinda la desigualdad entre conciudadanos que lo hagan partidos políticos que se llaman asimismo progresistas es mucho más extraño y confirma que realmente no pueden llamarse progresistas hoy quien defiende el concierto económico quien defienda el concierto económico o el cálculo del cupo

las críticas vienen por lo tanto a denunciar que nos encontramos ante un sistema excepcional aplicable únicamente a una parte del territorio nacional y que provoca desigualdad entre conciudadanos y una sobrefinanciación privilegiada de unos determinados ciudadanos

no aportamos lo que nos correspondería a la solidaridad interterritorial no tomamos parte de todos los instrumentos que deberían garantizar

entre los ciudadanos y esto ustedes lo saben perfectamente por lo tanto quien defienda posiciones contrarias a esto que estoy planteando sabe perfectamente que está mintiendo el sistema de concierto económico genera por lo tanto una enorme

de territorios españoles lo que supone una violación flagrante del principio de igualdad recogido en distintos artículos de la constitución española por otro lado si según ustedes defensores del concierto económico si el concierto económico según ustedes es tan justo

tan igualitario si efectivamente no rompe la igualdad si es un método eficaz

si es tan positivo para los ciudadanos por qué se le niega al gobierno de cataluña o se le negó en su momento al gobierno de cataluña un sistema semejante por qué se dice y se explica por activa y por pasiva que

de este mismo sistema a otras comunidades autónomas y en concreto a cataluña convertiría el estado absolutamente inviable

inviable y sin embargo se defiende aquí justo lo contrario hay quien dice también que son nuestros derechos sin embargo cuando dentro de un estado hay derechos que solo los disfrutan algunos ciudadanos no son derechos privilegios y esto no es desenfocar nada sino decir la verdad y por lo tanto efectivamente este sistema genera conflictos agravios comparativos quejas desconfianzas y mucha polémica y por lo tanto lo que proponemos nosotros es cambiarlo cómo a través de los instrumentos establecidos en la moción que nosotros hemos presentado

es instar al gobierno vasco a promover en primer lugar una aplicación correcta y transparente del sistema de concierto económico siguiendo los principios constitucionales consagrados

de la igualdad y para ello lo que planteamos es que en primer lugar se procederá al cálculo correcto transparente y solidario del cupo vasco de modo que se valoren correctamente las competencias estatales no transferidas y se incluya de acuerdo con su verdadero peso la participación de euskadi

interterritorial y en segundo lugar se revisarán con la máxima transparencia los parámetros de los impuestos indirectos y especialmente los ajustes por iva de tal forma que euskadi

en función de su consumo real y por otro lado lo que proponemos llevar a cabo a partir de cuanto antes porque creo que es ir al fondo de la cuestión

impulse todas las reformas legales y constitucionales que sean necesarias para promover un estado federal

y solidario donde este tipo de sistemas absolutamente anacrónicos que provocan desigualdad desaparezcan el objetivo por lo tanto es garantizar la progresividad la igualdad la equidad esto es lo que en definitiva nosotros
defendemos amaitzen joan maneiro jauna esto es lo que creo que debería defender cualquier

se trata de blindar la igualdad y tengo que decir para terminar que para mí es un verdadero honor poder decir estas cosas en el parlamento vasco
me siento muy orgulloso de defender estos principios amaitzen joan maneiro jauna me siento muy orgulloso de decir la verdad a la ciudadanía a todas las mentiras que ustedes van a plantear en este debate gracias eskerrik asko maneiro jauna egibar jauna zurea da hitza

esaten duenean cuando la fuerza causa estado la fuerza es el derecho

pero no se cumple bigarrena zen salbuespen militarra

antes me refería al decreto ley de julio del treinta y siete señor maneiro puede usted repasar leer

en julio del treinta y siete francisco franco y se verá identificado

notorio privilegio agravio para las restantes regiones cómo se ha respondido o no se ha correspondido a la generosidad excepcional

provincias traidoras la motivación es la misma orduan non dago diferentzia dónde está la diferencia que en este momento el concierto económico está asociado al autogobierno

del período inicial del señor canovas evidentemente ahora no no existe esa

el concierto económico asociado al autogobierno pero claro esa adecuación también necesita de nuevos acuerdos no sea que ocurra pues como dijo ayer el presidente del gobierno

en estos momentos no veo oportuno hablar

y del convenio en estos momentos y en otros sí horregatik esan denean kontzertu ekonomikoak behar duela baita ere

y en estos momentos esaten duen bezala batek pues igual en otros momentos y en otro contexto alguien puede tener la tentación de atacar ya directamente al concierto económico y al convenio por lo tanto que no se nos quiera aplicar aquello de no arriesgues en política ni mucho ni poco no sea que pierdas lo que tienes que ese es el mensaje de fondo que se está transmitiendo

no sea que pierdas lo que tienes y yo creo que eso es

este parlamento tiene que rechazar unánimemente porque no estamos hablando de ningún privilegio estamos hablando históricos de los territorios forales y si alguien tiene alguna otra duda en la medida en que en el contexto de cómo rediseñó cánovas todo esto

haber vencido en la guerra carlista también la propia constitución española tiene una derogatoria

se olvida la derogatoria segunda que habla de la derogación de las leyes

por lo tanto si se deroga una ley abolitoria se supone

que aunque sea en el tiempo y en el espacio con la distancia que media nos situamos en otro escenario horregatik

muchas gracias señora presidenta señor maneiro yo estoy muy orgulloso de que usted pueda bajar aquí y decir lo que quiera y ni siquiera lo consideraré un ataque al concierto económico siempre ha habido gente en contra del concierto económico y siempre habrá gente en contra del concierto económico otra cosa es que usted no se entere de lo que es el concierto económico

el sistema autonómico en españa no tenga ni idea de que desde hace casi diecisiete años todas las comunidades autónomas tienen competencias fiscales por ejemplo en el irpf

ninguno por ya no hablar de los impuestos municipales otra cosa es que usted no se entere de nada y venga aquí a hacer un discurso

pero por lo menos un poquito de rigor es un sistema beneficioso sí es beneficioso cuando crecemos más que el resto de españa

y es perjudicial si crecemos menos que el resto de españa porque como las competencias no transferidas se incrementan nuestro cupo se incrementa y nuestros ingresos son menores no sé si lo ha entendido pero bueno yo se lo intentaré

cuantas veces haga falta y es un sistema basado en la lealtad la lealtad institucional

de los territorios con el gobierno central que es algo que a los de esta bancada se les olvida permanentemente

y yo no le voy a decir mucho más simplemente decirle que usted no es el único que en esta cámara ha hablado en contra del concierto económico porque los antecesores de estos señores se han pasado veinte años

hemos tenido varios pero ya que

un poco de la historia yo creo que sí conviene hacer un poco de historia y el acuerdo del primer concierto económico no fue un acuerdo entre vencedores y vencidos

o qué pasa que los liberales que estaban en esas diputaciones forales eran vencidos o habían sido vencedores vamos a ver entonces

no fue un acuerdo entre vencedores y vencidos fue un acuerdo entre vascos con el gobierno de españa los vascos que estaban allí que por cierto hasta treinta años después de su viaje a barcelona no apareció el señor sabino arana planteando otras cosas es decir entre los vascos que estaban allí que por cierto eran tan vencedores como los liberales contra los carlistas en aquella tercero

digo para que queden las cosas claras porque es que a veces parece que nos reinventamos la historia de este país

y usted nos dice la diferencia de hoy

pues la diferencia de hoy con aquello y con aquella primera prórroga porque caducaba el concierto económico después del plazo establecido y fueron allí los tres diputados generales

y consiguieron la prórroga y a partir de ahí esas prórrogas fueron mejorando

y siguieron más o menos hasta nuestros días con la diferencia del lapso del periodo franquista en bizkaia y en gipuzkoa como usted ha señalado antes y la diferencia hoy cuál es pues hemos firmado una transaccional pero cuál es la diferencia

cuando usted dice que la constitución deroga la ley abolitoria

y la diferencia hoy es que el concierto económico está amparado en la constitución española y de desarrolla como los derechos históricos en el estatuto

con hace ciento cincuenta años y hoy esa es la diferencia lo que no entiendo es por qué ustedes se empeñan ahora en no reconocerlo

pero eso es así eso es así y cuando estamos hablando de lo que se habla y de los riesgos y de los no riesgos

vamos a ir a los últimos veinte para ver qué pasado en este país con el concierto económico

pues por ejemplo a la ley treinta y ocho barra mil novecientos noventa y siete

que se reforma el concierto económico de una forma sustancial tan sustancial tan sustancial que sobrepasa al propio estatuto de autonomía como usted bien sabe

el segundo concierto o el nuevo concierto porque había disposiciones en el estatuto de autonomía que prohibían concertar los impuestos especiales

y usted lo sabe y sin embargo se hizo es decir aquí cuando hablamos de que se cercenan las competencias del estatuto de autonomía en unas materias

por ejemplo en esta materia en la fiscal en la de los ingresos desde el año noventa y siete se superó el concierto se superó

y luego tenemos otro hito importante y usted lo ha señalado antes el famoso ecofin verdad

caducaba el concierto económico había un acuerdo para renovarlo y mejorarlo entre las diputaciones

torpedeó ese acuerdo y dejó tirado a los tres diputados generales en madrid

creo recordar los dejó allí tirados

uno de dos encima un gobierno con capacidad fiscal

cero porque es como usted muy bien ha dicho de los territorios históricos

se planteó la prórroga del concierto vigente oiga yo no he visto mayor ataque al concierto económico que votar

a la prórroga del concierto económico no he visto nada semejante nada semejante y quién aprobó la prorroga y por qué siguió vigente el concierto económico

y seguimos nuevo concierto económico dos meses después evidentemente sin el ecofin

pero claro como estábamos en la época del plan y lo importante era lo importante y lo importante era decir que nos quitaban el concierto económico y lo importante eran esas otras cosas en ese plan la palabra concierto económico no existe

el plan del señor ibarretxe se cargaba el concierto económico ya no existía ya no existía eso fue así y posteriormente hemos tenido y es muy reciente porque ha sido hace escasamente un año la ley siete barra dos mil catorce de veintiuno de abril de modificación del concierto económico oiga ustedes al señor montoro le tenían que hacer un monumento si son de verdad tan defensores del concierto económico porque

declarando la vigencia sin tiempo y el que ha hecho la última reforma todavía concertando nuevos impuestos especiales que se habían creado

si de verdad están ustedes por la labor de defender el concierto económico tal y como está y tal y como subsiste yo les emplazo a que le hagan un monumento al señor cristobal montoro porque no conozco a nadie

y en cuanto al cupo es evidente que los problemas que tenemos devienen también de esa época porque alguien tuvo la brillante idea de hacer una modificación en la ley del cupo y esa modificación

a que desde el país vasco se pudiera reclamar dinero al gobierno de españa por competencias que ya tenemos

con el sistema del concierto económico porque nuestras competencias las financiamos nosotros nosotros con el cupo pagamos las que no tenemos entonces

cómo es posible que alguien tuviera esa brillante idea y es lo que da lugar

y aquí el partido socialista tiene mucha culpa no se hagan las liquidaciones y digo que tienen mucha culpa porque la aprobaron ustedes esa ley del cupo y porque han estado en los dos gobiernos a la vez

y esa ley que ustedes aprobaron del cupo con el señor ibarretxe y con el partido nacionalista vasco dio lugar a esas discrepancias que hoy subsisten y cuando estuvieron en los dos sitios

no lo arreglaron y nosotros sí entendemos que también hay que hablar de estas cosas y explicarlas bien

y en el riesgo unilateral sí y a veces salimos perjudicados sí y tendremos que ajustarnos como todo el mundo

pues luego les diré algunas cositas más pero yo creo que si de verdad todos estamos de acuerdo en defender el sistema del concierto económico

cuando todos los partidos que están aquí salvo el nuestro proponen una reforma de la constitución que es la que ampara el concierto económico

incluidos ustedes es evidente que si se abre el melón

será lo que decidan los que lo tienen que hacer eskerrik asko damborenea jauna

ibilbide horri dagokiona izango da desde la defensa del concierto ninguna renuncia a la soberanía plena ese es el mensaje que eh bildu quiere trasmitir en el día de hoy

algunos de los que hoy aparecen como defensores son los principales enemigos del estatuto y por lo tanto del concierto los principales responsables de no hacer efectivo lo prometido de no cumplir con lo que nos asiste y con plena probabilidad de que mañana seguirán haciendo lo mismo tal y como lo han hecho durante treinta y cinco años de gobierno de felipe gonzález josé maría aznar rodríguez zapatero y mariano rajoy

los principales responsables de un agravio que ya se alarga durante treinta y cinco años un agravio para más inri con celebración

sino de proyectos políticos se puede entender que el concierto el estatuto el autogobierno

como punto de soldadura que nos une a españa o

hacia la construcción de un estado vasco euskal herria bildu se sitúa en la segunda opción sería interesante aclarar dónde se sitúa cada uno si en la estación de llegada o en la estación

egindako erasoaren egindako agrabioaren ondorioa da por lo tanto euskal herria bildu defensa del concierto sí pero no a la defensiva no nos podemos quedar en que no nos quiten

el estado hace tiempo que nos ha tomado la medida el ataque el ataque a lo que ya tenemos es la forma más efectiva de que no avancemos

entendemos que al pnv le resulte cómodo este debate

en euskal herria bildu lo planteamos en términos de cómo dejamos de ser sucursal y aprovechar para ello todos los recursos a nuestra disposición

falso mentiroso patrañero como solo había hablado yo entiendo que iban dirigidos a mí porque no había tomado nadie la palabra hasta ese momento

esos apelativos verdad porque además usted creo que confunde y creo que se lo debiera de hacer mirar la igualdad con la uniformidad son dos cosas absolutamente distintas

uniformes porque existen singularidades por mucho que usted no lo quiera reconocer existen y eso no es incompatible con la igualdad de derechos y si ha habido declaraciones de presidentes de comunidades autónomas y responsables políticos del partido de algunas comunidades es por un tema muy concreto porque se encuentran en una situación

porque le voy a decir una cosa aunque el cupo vasco fuera el doble el doble de lo que es en este momento eso no resuelve el problema de financiación del resto de comunidades autónomas españolas son otras medidas como la equiparación fiscal con europa las que aportarían los ingresos necesarios yo en cualquier caso quisiera quedarme con lo positivo que resulta que hoy seamos capaces de salir de aquí con una votación al menos nominal

no parece que sea realmente sincera en la enmienda que hemos pactado al menos los firmantes compartimos la defensa del concierto económico

y yo creo que hay que hacer política con los instrumentos de autogobierno que tenemos pero lo que no creo es que eso sea

construir mitos y leyendas leyendas soberanistas aprovechando esos instrumentos no convirtamos

con el estado porque el concierto y el cupo son importantes para euskadi por varios motivos entre ellos porque la mayoría de los vascos la inmensa mayoría

para su vida y porque con el paso del tiempo el concierto se ha convertido en un elemento de gran significación política

a nuestro autogobierno y con el que se identifica a la sociedad vasca y más allá del mito

hay que destacar que el paso fundamental para consolidarlo lo que en mil ochocientos setenta y ocho fue una fórmula transitoria de inserción se decía en el concierto económico español fíjese usted en la literatura

y con la constitución española ahí se produce el paso fundamental porque son estos dos elementos el estatuto y la constitución los que le dan al concierto rango de ley permanente

se ha desarrollado muchísimo desde entonces por lo tanto es bueno que hablemos de realidades y no de construcciones míticas y usted señor urruzuno sinceramente creo que se ha equivocado de debate creo que le han podido las prisas supongo que se ha metido un chute con la locura

y como ya han presentado ustedes una solicitud de pleno monográfico para hablar del derecho a decidir pues quizás este discurso un poco fuera de tono y de lugar correspondería entonces

hablando un poco del concierto deslizamos nuestra doctrina soberanista desde luego a nosotros no nos podrá usted acusar de falta de claridad en nuestra propuesta

nosotros defendemos el autogobierno y la profundización del mismo no defendemos ni vamos a defender ni vamos a apoyar

a ninguna política que proponga la ruptura con el resto de españa para que no haya ninguna duda si es que había alguno y ustedes tienen legitimidad para reclamarlo

de los intereses de todos los vascos por lo tanto cuando llegue ese debate que no eraeste ya lo discutiremos con la profundidad que sea necesario establecer

con el convencimiento la mayoría de los que estamos aquí de que hoy hemos puesto una pequeña

conseguir y no se trata solamente de que cada cual haga en su casa lo que debe que también y dios en la de todos

o no es importante que también el gobierno vasco las diputaciones los ayuntamientos los partidos políticos hagamos esa labor de pedagogía también dentro también dentro del país vasco

sino como quisieran que fuese por lo tanto aprovechemos el día de hoy saquemos de positivo lo que tiene que una inmensa mayoría de los parlamentarios representados aquí vayamos a hacer una declaración expresa de apoyo al concierto

un horizonte de futuro que para nosotros es el de la mejora de las condiciones de vida de los vascos y no otros eskerrik asko pastor jauna maneiro jauna zurea da hitza

sí gracias presidenta a mí me hace gracia esto de que hay que hacer pedagogía

me suena a que lo que se pretende es que hay que defender el pensamiento único

es mejor no hablar del asunto y que es preferible que se diga a sus representantes fuera de euskadi en este caso a los del partido popular y del partido socialista oigan no hablen del asunto no incordien no vaya a ser que se enteren de lo que hay encima de la mesa yo creo que esta es la pedagogía que ustedes

en los medios de comunicación yo creo que no debería haber ningún tipo de problema para que ustedes presenten sus argumentos en relación a la defensa del concierto económico más allá de decir

constitución española cosa que ya sabemos pero ustedes tienen la oportunidad incluso a través de artículos de opinión para plasmar efectivamente cuáles son los argumentos que digan si efectivamente este sistema es igualitario y es solidario

es solidario con el resto de ciudadanos españoles no no lo es se rompe la igualdad como consecuencia de que este sistema se aplica únicamente a dos comunidades autónomas

por lo tanto eso es lo que ustedes tienen que intentar argumentar si es que pueden pero parece que no hace unos días un periódico

en relación a esta cuestión es muy interesante lo que decía el señor

que somos solidarios que de nuestras finanzas no se derivan perjuicios para terceros

en este texto que fue publicado en un medio de comunicación todos decían básicamente lo mismo partido nacionalista vasco bildu

y partido popular todos detrás del pensamiento único y en defensa del concierto económico incluso podemos también a favor

a favor de que nada cambie a favor de dejar las cosas como están a favor del mantenimiento de determinados privilegios

de ciudadanos porque cuando hay unos derechos supuestos que pueden disfrutarlos unos ciudadanos pero otros ciudadanos de ese mismo país no pueden disfrutarlos esto

y ustedes lo saben perfectamente bien el señor damborenea siempre me dice básicamente lo mismo usted no se entera de nada tampoco se entera de nada

ni carlos monasterio ni ángel de la fuente ni ruiz soroa

ni todos sus dirigentes que están haciendo política fuera de euskadi nadie sabe nada en relación a esta cuestión nadie entiende nada vamos a ver por ejemplo qué era lo que decía hace diez días el catedrático de hacienda

a este sistema cuando le preguntaban lo que paga euskadi de cupo es

en la práctica no obstante esto se ve minorado parcialmente porque algunos componentes del sistema están medidos de forma incorrecta y tienden a favorecer a euskadi en todo caso incluso el cupo teórico daría lugar a una aportación a otras comunidades autónomas mucho menor que lo que hacen las comunidades ricas de régimen común

generalizar el sistema foral es imposible decía ignacio zubiri las comunidades pobres perderían muchos recursos incluso limitarlo a cataluña sería inviable política y económicamente qué era lo que decía ángel

el problema es que el cupo es sustancialmente más bajo de lo que debería ser aplicado incluso aplicando los criterios que fija la propia ley del concierto económico

si el cupo estuviese bien calculado la fórmula sería en principio generalizable

que no podría recaudar impuestos en ninguna parte de su territorio todo esto decía y decía también ángel de la fuente que todos nos sentimos únicos y seguramente lo somos efectivamente pero eso no nos da más derechos que a otros ciudadanos y el propio señor

privilegiado de obtención de recursos financieros decía hace diez días

a ustedes parece ser que les asesora para la reforma constitucional euskadi contribuye al fondo de compensación interterritorial que en la constitución parecía llamado a ser el fondo de interterritorial pero ese fondo ha quedado como algo casi residual la nivelación o solidaridad interterritorial

de otros fondos a los que no contribuyen el país vasco y navarra más claro por lo tanto

federal y extenderlo a cataluña si lo extendiéramos cosa que es imposible haría estallar

no se entera absolutamente de nada amaitu mesedez se trata en definitiva sí termino es que son cosas importantes y al fin y al cabo se nos ha reducido el tiempo

en fin yo lo que pretendo es dar argumentos y nuestro objetivo es defender la solidaridad y defender la igualdad no es atacar nada en concreto sino defender la igualdad

para lo cual evidentemente hay que impulsar todas las reformas legales que sean necesarias incluida evidentemente la reforma de la constitución española esto es lo que creo que debe hacerse y lo más importante en política y la mejor forma de regenerar

y la propia democracia es decir la verdad y decir las mismas cosas en el parlamento vasco en la asamblea de madrid en murcia o en cataluña digan

lo hacemos sin temor ni temblor gracias eskerrik asko maneiro jauna

pena de falta de tiempo que no le ha permitido hacer esa alusión o contestación sobre francisco franco y la motivación de su decreto ley

la misma señor damborenea cuando estábamos hablando de

vencedores y vencidos evidentemente la apuesta de vascos

por los carlistas no era una situación o una disputa dinástica la que se estaba jugando aquí sino quién iba a defender

la vigencia de los fueros porque en aquel momento también como en otros tiempos también se da siempre existió la figura de los fueros buenos

como en todas las épocas y lo que en aquel momento sucede es que efectivamente lo que puede ser el aspecto económico del concierto económico pero si se sacrifican todos los contenidos políticos entonces esa es la diferencia

las fórmulas de actualización y yo creo que en un anterior debate también reconocía lo que pueden ser esos signos de fragilidad que está

porque no tiene en ese esquema de bilateralidad las garantías necesarias o precisas porque evidentemente

no hay imposición hay nuevos impuestos efectivamente tienes que adaptar y tiene que entrar de forma concertada el acuerdo entre las dos instituciones

porque sí le falta al concierto un mecanismo que le obligue a negociar en este caso con el país vasco o con navarra

todas las circunstancias desde la concepción de un concierto completo por eso cuando hablamos también de la presencia directa en el ecofin estamos hablando de lo mismo

que haya ido en una dirección contraria o de cuestionamiento al concierto económico ni el convenio navarro y la experiencia demuestra que todos los acuerdos que los territorios históricos y también el gobierno vasco con el gobierno español automáticamente detrás han venido las instituciones navarras o la institución navarra

por lo tanto estamos en la cabecera de la responsabilidad de la adaptación de la figura del concierto económico baina nik aitortzen dut

no vamos a cuestionar esto pero en otros momentos quizás sí y hay que sacar de esa inseguridad al concierto económico y eso sí es cuestión de voluntad política y ha cometido errores en su exposición

en el que parece que el partido nacionalista vasco hace deshace rompe ha citado el hecho de que

del dos mil cuatro el nuevo estatuto político citando usted a ibarretxe dice que se cargó la figura del concierto económico si es la piedra angular del nuevo estatuto político no se lo han leído o sea aquello que votaron que no ni siquiera se lo han leído pues lea usted

el artículo cincuenta y cinco donde se establecen las relaciones entre las instituciones vascas y el gobierno o las instituciones del estado

y verá como se plasma en el centro de gravedad política

el concierto económico y se habla y se menciona la necesidad de la comisión mixta entre las instituciones no no para el concierto económico evidentemente para el cupo

por el acuerdo o porque hemos suscrito cuando menos un texto

campamento base pero que inequívocamente entiendo todas formaciones políticas o grupos vamos a defender y espero

esto que hemos suscrito por lo menos tres ya veremos a ver cómo se plasma la votación que sea también un mecanismo

muchas gracias señora presidenta señor maneiro es que usted lo confunde todo confunde derechos

derecho será a pagar impuestos y a recibir servicios no

qué más le da usted que le cobre el ayuntamiento la diputación la comunidad autónoma el estado o bruselas

el derecho es a ver quién me cobra y de todos esos señores que usted cita

algo de razón y otros ninguna y yo ya le he dicho que el cupo hoy está mal medido y le he dicho por qué lo he dicho en mi primera intervención porque hubo una modificación en la última

y nosotros nos abstuvimos nos abstuvimos porque rompía los criterios del concierto económico y ha pasado lo que ha pasado señor

estoy de acuerdo con usted cuando le dice al señor maneiro que confunde igualdad con uniformidad por favor retiren

hacen exactamente lo mismo con el concierto económico que todo tiene que ser igual

si eso es el sentido de armonización tampoco confundan ustedes igualdad con uniformidad ni armonización con uniformidad

y qué ocurre si el gobierno vasco no quiere hacerlo como ocurrió en la renovación del concierto económico

entonces desaparece el concierto económico y entonces si el gobierno de españa dice pues yo lo prorrogo y no desaparece el concierto económico lo ponen a parir votan en contra unilateralidad

quién dijo pues yo me lo descuento porque sí quién empezó con esa historia

esto nos lo descontamos porque sí y al señor ministro de aquellos diciendo pues ahora yo descuento de aquí

esto de claro cuando dos se tienen que poner de acuerdo por qué parte usted de la base de que siempre es uno el que se opone oiga hasta donde yo he visto cuando ha gobernado el pp no ha habido ningún problema y le he hecho el relato y le he hecho el relato

pues depende porque el estatuto de autonomía sigue diciendo que no pero como estamos todos claro como estamos todos de acuerdo

y porque además es lógico porque hay cosas en el estatuto que se hicieron hacer que yo no sé por qué se hicieron

por ejemplo me dice usted qué el plan ibarretxe contemplaba el concierto económico por favor el plan ibarretxe

del plan ibarretxe que citaba la palabra concierto económico

dice la comisión mixta isiltasuna la comisión mixta estaba prevista para el caso de que haya un acuerdo en el que haya que pagar

con el proyecto del estatuto catalán y con el concierto que teníamos y vi perfectamente las diferencias que había entre unos otros y los de más allí y lo geta que eran algunos de más allí

que no es el del concierto precisamente miren yo creo que está muy claro que el concierto económico le irá muy bien

primero si el partido nacionalista vasco deja de hacerse una apropiación indebida del tema y lo va vendiendo como suyo porque evidentemente

no sé si son conscientes pero bueno eso ocurre es bastante normal y le diré que el concierto económico le irá bien

si el partido popular y mariano rajoy siguen siendo presidentes del gobierno de españa porque en caso contrario

diciendo que hay que cambiar la constitución pero nadie dice cómo

y los que lo quieran abrir si tienen votos sabrán como lo cierran pero no nos echen la culpa a los demás

voten todos al partido popular dentro de dos meses eskerrik asko damborenea jauna

lo que pretendía decir señor pastor es que cuando menos resulta chocante

no ya respecto a la unidad de españa en eso tranquilo que no me

lo que me crea más duda es cuando vosotros situáis el concierto el autogobierno el estatuto una vez

lo situáis en términos de solidaridad de servicios públicos de gasto social

y yo le diría a qué ha destinado el gobierno del partido socialista obrero español esos

euros por persona que pagamos los vascos y vascas en concepto de cupo al estado

lo que veo es por ejemplo dos mil diez septiembre

reforma laboral premio a la patronal palo a los trabajadores dos mil once julio

reforma de las pensiones más palo a los pensionistas y luego ya

de la constitución primero ángela merkel y los bancos y luego ya si eso

entonces a qué viene ahora eso de que solidaridad gasto social servicios públicos y luego llegan los señores de la derecha llegan al gobierno de españa

ya les ha hecho ya el partido de la izquierda y no les queda ya más que empujar en esa misma dirección y eso es lo que vosotros queréis ocultar en estos debates así que menos

dejémonos de solidaridades de gastos sociales de servicios públicos y apuntemos el debate a lo que respecta esan nahi duguna da

baina ez dugu geratzen zaizkigun eskumenen kontrako erasorik ere onartuko solo existe una manera de superar esa subordinación

de país conocer la voluntad de la ciudadanía y en esa medida implementar iniciativas para hacer cumplir esa voluntad mayoritaria

para eso los acuerdos deben de ser entre quienes reconocen a este pueblo

decía cuanto más obedécimos peor nos trataron eta uste dugu

muchas gracias señora presidenta yo no no quiero extenderme mucho en este punto porque me parece que es un tema bastante obvio

acabamos de hablar hace un momento del concierto económico y de la ley del cupo y ahora toca hablar de la ley de aportaciones

entre las instituciones vascas de ese dinero que se recauda de todos los vascos llevamos un retraso de cinco años como decía hubo un intento no hace mucho

de plantear una reforma de esa ley de aportaciones con escaso éxito con escaso éxito todas las diputaciones

que es urgente llegar a un acuerdo y yo por citar solo a algunos

diré que el señor diputado general de bizkaia el día de su toma de posesión dijo

llegar a esa ley de aportaciones bien es verdad que después de reunirse con el lehendakari dijo

se retrasará hasta el dos mil diecisiete por lo menos hemos visto declaraciones hemos oído declaraciones del nuevo diputado general de álava pidiendo una nueva ley de aportaciones y básicamente en el mismo sentido que el anterior diputado general de álava porque dice

y hemos visto declaraciones del diputado general de gipuzkoa que también dice lo mismo y curiosamente ninguno de los tres

que hay que esperar a que se llegue a un acuerdo con la ley del cupo porque es evidente que no hace falta que es la única excusa que nos dio el señor consejero el otro día para decir que todavía no había que traer o no había que trabajar en una nueva ley de aportaciones

porque ni siquiera ya es un tema de partidos ha habido partidos diferentes gobernando las tres instituciones forales en los últimos cuatro años

en las cuatro antes se podía alegar es que era muy difícil ponerse de acuerdo parece que será más fácil que el partido nacionalista vasco se ponga de acuerdo consigo mismo

evidentemente cumpliendo los trámites que establece el estatuto y la lth en fin que podamos tener y podamos discutir en esta cámara

nueva ley de aportaciones que regula y fije cuáles son de verdad esas aportaciones cómo deben ser de verdad esas aportaciones y cómo se hace más justo el sistema tanto para el gobierno vasco pero también para las diputaciones y los ayuntamientos

ya no proponemos nada no estamos en ningún sitio cuando estábamos propusimos no se nos hizo ni caso vale ahora que están ustedes propongan algo y desde luego no se excusen

en una excusa muy barata esta de decir es que hay que esperar a la ley del cupo la ley del cupo también es cosa de dos

y si no se reúnen porque el gobierno vasco no quiere y cuánto tiempo vamos a estar así

la ley del cupo con la ley de aportaciones y nada es nada porque las aportaciones son después de descontar el cupo

establecer un sistema más justo y no un sistema como el que se estableció que empezó creando un fondo de solidaridad porque ya sabía que era injusto desde el minuto uno

debieran de ser ustedes capaces de ponerse de acuerdo consigo mismo y traernos un proyecto de ley a esta cámara eskerrik asko damborenea jauna

sí gracias presidenta nosotros ya hace año y medio en concreto el día veintiuno de febrero de dos mil catorce interpelamos al

cuestión en relación con el sistema actual de reparto de los flujos de dinero entre las distintas instituciones vascas que establece la actual ley de aportaciones y sobre la necesidad de actualizar dicha ley y presentarla cuando antes parlamento hace ya más de un año en marzo de dos mil catorce y efectivamente seguimos sin tener esta ley de aportaciones y me da la sensación de que efectivamente el gobierno el consejo vasco de finanzas no va a presentar esa ley de aportaciones en este parlamento

en este parlamento es posible que no hubiera la mayoría suficiente para sacarla adelante pero en todo caso veremos los argumentos del partido nacionalista vasco en relación a esta cuestión

por iniciativa propia en primer lugar tiene que haber un acuerdo por mayoría en el consejo vasco de finanzas tampoco la cámara tiene esa capacidad para la iniciativa legal ha de esperar a que el consejo vasco de finanzas tome un acuerdo y después se tramite aquí esa ley por un procedimiento

y decía hay que conseguir mayoría absoluta entre las instituciones y somos cuatro instituciones de tres colores políticos distintos esto decía en marzo de dos mil catorce pero ciertamente las cosas han cambiado y el partido nacionalista vasco controla todas las instituciones por lo tanto no debería haber ningún tipo de problema para que esa ley de aportaciones se presente cuanto antes pero también añadía

ziurtagarria si en la cámara vemos que no tenemos mayoría para aprobarlo y eso también lo debemos tener en cuenta es decir que quizás por lo tanto en este caso

adelante y decía también que las cuatro instituciones hemos empezado a analizar las consecuencias y las influencias de la ley de aportaciones

analizando decía hace año y medio y señalaba una serie de criterios para defender de cara a la elaboración de esta ley nos exige decía un trabajo a fondo y en eso estamos trabajando y por ese camino

meses y efectivamente el gobierno no ha presentado nada apenas unos días antes había sido posible cerrar un acuerdo en el consejo

cerrar el ejercicio fiscal de dos mil trece y fijar definitivamente las aportaciones de las diputaciones a las arcas del gobierno vasco en aplicación de la ley de aportaciones el acuerdo

que solucionaba el desequilibrio generado en el reparto de los ingresos recaudados

por la actualización de balances y que por cierto ponía encima de la mesa que esta ley de aportaciones es muy mejorable y que posiblemente contenga imprecisiones técnicas o problemas técnicos que supongo yo habrá que solucionar

días después de aquella interpelación el diez de marzo de dos mil catorce el consejero defendía hacer ajustes efectivamente en la ley de aportaciones para que todos los territorios históricos

dos mil catorce se consensue el ajuste de la ley

y la ley de aportaciones sigue prorrogada lo que por cierto en nuestra opinión evidencia también

el fracaso de las diputaciones forales o de algunas de ellas o de una de ellas sino sobre todo lo que evidencia todo esto es el fracaso del modelo institucional vasco del sistema que tenemos

en nuestra enmienda además de defender como decía el señor damborenea algo obvio es decir pedir al gobierno que presente esta ley cuanto antes

lo que planteamos también es impulsar los cambios legales y constitucionales que sean necesarios para cambiar todo este estado de cosas y este lío monumental

entramado institucional vasco y por eso además de decir que sí

el grupo popular lo que décimos es que hay que además impulsar una serie de reformas para modernizar el conjunto del país que por cierto

idéntico al segundo punto defendido en el punto anterior porque está todo relacionado consejo vasco de finanzas concierto económico ley del cupo entramado institucional

lo que planteamos en ese segundo punto es que se impulsen las reformas legales que sean necesarias para ir hacia un modelo de estado realmente federal igualitario

raciocinio al conjunto de las instituciones españolas y en este caso también de las vascas en fin esta es por lo tanto nuestra enmienda de totalidad ignoro si el resto de grupos van a votar a favor de la moción del partido popular

para que presente esta ley de aportaciones cuanto antes gracias eskerrik asko maneiro jauna

eredua porque la ley de aportaciones viene siendo objeto de debate

el año pasado fue especialmente relevante por la distorsión generada por la recaudación por la actualización de balances pero no fue nada nuevo todos recordamos y podemos recordar desacuerdos en años anteriores que se han saldado con acuerdos puntuales

pero en otros casos no se ha habilitado ninguna solución correctora y la realidad es que la aplicación de esta ley viene siendo problemática desde hace demasiados años diferentes informes técnicos vienen subrayando los desequilibrios y desajustes que genera la aplicación de esta ley y apuntan a que hay un territorio

que contribuye a la financiación de las instituciones comunes por debajo de su capacidad recaudatoria y respecto al fondo general de ajuste han sido gipuzkoa y araba

no les ha permitido a ninguno de ellos cumplir el objetivo de que su participación relativa en la recaudación alcance el noventa y nueve por ciento del coeficiente

se trata en definitiva de dotarnos de una nueva ley de aportaciones que no haga un simple seguidismo del anterior sino que evite los desequilibrios y perjuicios
mutuos que esta genera eskerrik asko eskerrik asko pinedo andrea

el partido popular nos propone mediante una proposición no de ley que se encargue al gobierno el que se traiga aquí una nueva ley de aportaciones

yo lo primero que quiero decirle porque he estado muy atento a su intervención es que

la propuesta que hace ni la proposición no de ley ni tan siquiera su intervención aquí aclara nada en relación con lo que usted se supone que tiene que perseguir

una cámara plural y por lo tanto no todos pensamos igual ni tenemos el mismo interés o los mismos intereses a la hora de hacer la política

quiere que haya una nueva ley de aportaciones será porque tiene algún objetivo al que quiere llegar y yo creo que esta es la exigencia mínima que hay que hacer en el trabajo legislativo y en el trabajo parlamentario cuando se proponen leyes nosotros creemos quetanto la ley de aportaciones como otras muchas

entramado institucional con nuestra forma de organizarnos yo creo que todas ellas

de ser revisadas y de ser mejoradas pero yo creo que hay que hacerlo haciendo propuestas que se puedan valorar y sobre las cuales podamos trabajar el grupo socialista en este periodo de sesiones en esta

ha planteado iniciativas legislativas ha planteado la ley de la vivienda ha planteado la ley de territorios históricos ha planteado otro tipo de políticas donde proponía lo que quería hacer

a la fiscalidad o por ejemplo nosotros venimos planteando desde hace tiempo a nivel de españa que es necesaria una reforma constitucional ir hacia un modelo federal qué es lo que querríamos cambiar esta es nuestra propuesta política este es nuestro planteamiento y nuestra forma de trabajar y por eso creo que es razonable que a ustedes les pidamos una correspondencia es decir para qué quiere el partido popular

una nueva ley de aportaciones porque lo que me parece bastante ilógico es que se le encargue a un partido concreto que está gobernando

que tienen que tratar sobre la ley de aportaciones que se le plantee sin darle ningún tipo de indicación que haga una ley como si la propuesta que pudiera hacer fuera a satisfacer los intereses del partido popular

otros mis objetivos políticos mis objetivos políticos

como usted no aclara nada y además aquí ha dicho reiteradamente que no propone nada pues hay que interpretarle y efectivamente en la interpretación y tirando de hemerotecas casi siempre lo único que aparece

álava está agraviada en relación a la aportación que hace al conjunto de la que se beneficia el gobierno vasco como si las aportaciones fueran un sistema para beneficiar a territorios o para beneficiar al país vasco en el sentido puramente

si la ley de aportaciones lo que tuviese que regular fuere solo qué parte de los recursos se llevan las diputaciones

y qué parte se lleva el gobierno esta guerra esta guerra esta especie de propuesta de guerra territorial esta especie de agravios comparativos este debate

hacia la ciudadanía nosotros no lo vimos razonable porque en realidad el gobierno vasco

y los ayuntamientos lo que tienen que hacer es garantizar la sanidad garantizar la educación garantizar las políticas sociales garantizar la inversión pública garantizar todos aquellos aspectos que tienen que ver con la ciudadanía

para saber cómo resolvemos todo eso sí estoy abierto a un debate para ver cómo a cada institución se le asigna unas funciones unas competencias y unos recursos para que les puedan ejecutar

a que no haya permanentemente un solapamiento de competencias o a que haya invasiones incluso de competencias o a que haya limitaciones de competencias yo sí estoy abierto a planteamientos

institucional de reforma de la administración que permitan que con el objetivo ciudadano con el objetivo de llevar a la ciudadanía mejores servicios públicos

establecer un mecanismo de organización que sea mucho más moderno más avanzado y sobre todo más solidario más justo más igual de mejor reparto más equitativo pero nada de esto se plantea en la propuesta que hace el partido popular el partido popular durante muchísimo tiempo viene diciendo pues que álava está mal parada y esto

de querer hacer batallas políticas desde aquellas trincheras

donde políticamente cree que le va mejor que realmente a solucionar algún problema político yo creo que la desigualdad en el país vasco no está entre un ayuntamiento una diputación y el gobierno la desigualdad en el país vasco está entre quien tiene empleo y quien no lo tiene entre quien tiene una renta pequeña y una renta

a servicios públicos y mucha más lejanía o más dificultad entre quien tiene unas mejores comunicaciones o unas peores comunicaciones para su movilidad hacer un debate en abstracto hacer un debate en el si el gobierno vasco

si la diputación foral de álava en vez de dieciséis tiene que pasar al catorce

oiga esto así sin más en frío sin hablar de las competencias sin hablar de lo que hay que garantizar sin hablar de las políticas

es que usted vaya a algún tipo de concreción a algún tipo de orientación si usted quiere una ley de aportaciones será para algo será para llegar a algún sitio

vasco le ofrezca en bandeja el menú que a usted le gustaría degustar porque seguro que no lo va a hacer

y entonces para qué hacer esta cocina si no es necesaria

la ley de aportaciones con independencia de que su actualización es una responsabilidad que compete a las instituciones concernidas y esto en la ley de aportaciones se establece con claridad cómo se hace con independencia de eso cuando venimos aquí

oiga asuma el riesgo de decir políticamente hacia dónde nos quiere llevar usted porque es que no ha planteado absolutamente nada es más ha hecho un alarde de que

nosotros no le encargamos al partido nacionalista vasco que nos hiciera la ley de vivienda ni la de territorios históricos

las hemos hecho nosotros ni la ley municipal ni unas cuantas cosas donde nosotros ya sabíamos qué es lo que queríamos y ya estábamos defendiendo

o estamos todavía en fase de debate parlamentaria pero sabiendo hacia dónde queríamos llegar por lo tanto en fin esta forma de trabajar quizás es muy cómoda para usted porque es encargar cosas al adversario pues bueno yo no sé interpretarla

no la comparto y por lo tanto no se la voy a avalar si usted quiere una modificación de la ley de aportaciones yo quiero saber qué quiere hacer usted

en una modificación de la ley de aportaciones veré que efectivamente hay un trabajo y que lo puedo valorar y sobre el cual me puedo posicionar

en este momento su iniciativa es una iniciativa absolutamente blanca es decir no tiene marca no tiene nada y quizás es peor se lo ha encargado al adversario en fin ya esto nos parece

mesedegarria no es condición sine qua non

conveniente que previamente a la aprobación de la ley de aportaciones aclaren las liquidaciones pendientes del cupo y también la nueva ley del cupo por qué porque la ley de aportaciones lo que hace es determinar cómo cómo se reparte el resto de la recaudación después de en primer lugar según lo establecido en la ley de territorios históricos

abonar la parte de cupo que tenemos que abonar al estado beraz damborenea jauna argi dago diru kopuru batetik

referencia para muchos ámbitos del estado y también de otros entornos europeos no se puede

afirma continuamente que es un sistema

para resolver las discrepancias que tenemos en torno a la interpretación del cupo usted ha hecho referencia a esa pregunta y la cuestión es esa pongámonos pongámonos a resolver las discrepancias que tenemos

y resolveremos aquellos problemas en primer lugar y tendremos después una buena y nueva ley de aportaciones eskerrik asko eskerrik asko gorospe

muchas gracias señora presidenta hombre señor prieto

para hacer un pasemisí pasemisá y vamos a votar en contra porque es el acuerdo que tenemos con el partido nacionalista vasco y punto y entonces me dice es que es alucinante

con las ideas lo que yo propongo y tal sabe que no puedo hacerlo sabe que no puedo hacerlo no sí sí me lo ha dicho sí me lo ha dicho

no sabe usted lo que opinamos nosotros oiga debiera de saberlo nosotros no votamos a favor de la vigente ley de aportaciones dijimos que era injusta

y no tanto en los coeficientes horizontales que también y en el vertical

usted si quiere las aportaciones y las enmiendas que nosotros hicimos a esa propuesta a ese proyecto de ley de aportaciones

en su día yo no he venido aquí con la diputación de álava

usted y su partido gobierna en las tres diputaciones forales usted sí que puede claro usted sí yo no

llevar sus propuestas al consejo vasco de finanzas ya que está en los tres consejos de gobierno y además tiene el acuerdo aquí con estos claro estos están en los tres

es que las tres diputaciones se quejan las tres

en su toma de posesión del cargo era que inmediatamente iba a plantear la reforma de la ley de aportaciones

quince días después reunión con el lehendakari y donde dije

por qué porque las tres salen perjudicadas

y hay un beneficiado y porque el sistema no es de realidades es de previsiones

yo recibo siempre y los demás ahí se quedan claro ese es el sistema que tenemos es posible que usted esté de acuerdo

ya le digo nosotros no votamos esa ley ustedes sí a lo mejor usted

representante del partido socialista está de acuerdo con la actual ley de aportaciones le parece muy bien y usted entiende que no hace falta traer una nueva pero no me diga a mí que yo tengo que traer mis propuestas yo no puedo llevarlas donde hay que llevarlas ni discutirlas se lo dije en la legislatura pasada donde sí estábamos y la llevamos

y llevan reuniéndose desde el dos mil trece hasta hoy desde el dos mil trece

esta ley de aportaciones al principio y está claro que no va venir que no va a venir en esta legislatura

ahora tenemos tres diputaciones gobernadas por el pnv y por el psoe

una nueva ley de aportaciones y a qué esperan a que dentro de un año que a lo mejor hay otro gobierno entonces va a ser más fácil

mayoría absoluta no lo siguiente en esta cámara no se buscó

ese acuerdo ni se intentó pues hoy parece que es más fácil pues tampoco

ustedes sabrán porque ya le digo tan responsables como ellos son ustedes que están en los tres gobiernos forales y apoyan al gobierno vasco en esta materia y mire usted usted me dice que yo yo lo que no soy es desde luego soy bastante coherente y en esta vida

es complicado a veces pero procuro serlo entonces yo suelo cumplir las leyes y si a mí una ley me dice que esto me lo tienen que traer el gobierno vasco desde el consejo vasco de finanzas

y luego nos lo traiga aquí que es cuando yo puedo discutirlo yo ya sé que ustedes están en otra dinámica

bien nosotros vamos a seguir respetando la constitución el estatuto el concierto y la lth mientras esté vigente y cuando cambie

aquí y en las diputaciones a que hagan sus deberes donde los tienen que hacer

no sé si usted se ha enterado en los últimos cinco años las tres cabreadillas a ver si son capaces de encontrar un modelo

sí gracias presidenta me decía la señora gorospe que yo he venido a decir algo así como que esta ley de aportaciones evidencia el fracaso del modelo no he dicho exactamente eso aunque también es verdad he dicho exactamente que

es que ustedes no traen esta ley de aportaciones al parlamento vasco y que tengamos una ley de aportaciones prorrogada desde hace cuatro años esto es lo que evidencia

traer esta ley ya hace año y medio el propio consejero decía que estaban en el tema y que la traerían

era complicado porque las instituciones estaban en manos de diferentes partidos políticos eso ya no es así las instituciones están gobernadas por el partido nacionalista vasco y por el partido socialista de euskadi si se quiere por lo tanto

el propio calendario legislativo o lo que sería la obligación del propio consejo vasco de finanzas de traer esa ley de aportaciones esto es por lo tanto lo que evidencia el fracaso del modelo

ustedes mismos son incapaces de cumplir las exigencias que están incluidas dentro de ese modelo que tenemos pero lo que yo planteo es mientras este cambio de modelo no se lleva a cabo efectivamente lo que hay que hacer es pedir otra vez al consejo vasco de finanzas que traigan esta ley de aportaciones ustedes antes decían que el problema era que las instituciones estaban

no tenemos una ley del cupo actualizada cosa que es también falso porque tal como se ha dicho no hace falta tener

para aprobar la correspondiente ley de aportaciones son excusas por lo tanto y evidentemente lo dijo también el propio consejero hace año y medio esta ley de aportaciones puede modificarse hay problemas técnicos se provocan

de asuntos en relación a que determinados territorios históricos puedan verse perjudicados nunca lo he hecho me he opuesto a ello pero evidentemente creo que ya han pasado bastantes años exigir al gobierno y al consejo vasco de finanzas que traigan esa ley porque efectivamente y también se me dijo desde hace año y medio por parte del consejero

no puede presentar esa ley evidentemente hay que impulsar reformas hay que reformar señor prieto la constitución

realmente federal y el federalismo es igualdad hay que ir hacia la reforma de la ley del concierto económico y lo hemos hablado antes y creo que he sido meridianamente claro

las juntas generales de los territorios históricos y las diputaciones forales en fin hay que hacer muchas cosas creo que soy bastante claro cuando hablo de estos asuntos pero mientras esto no se haga yo creo que lo razonable es que este parlamento pida al gobierno que presente su propia ley de aportaciones y esto es lo que se está exigiendo por eso

como una especie de excusa para apoyar otra vez al partido nacionalista vasco

está obligado el consejo vasco de finanzas a presentar esta ley sí o no sí

sí efectivamente tiene que presentarla qué propone usted que el señor damborenea incida en esa proposición no de ley en cuáles serían los criterios que el partido popular incluiría dentro de esa ley de aportaciones se nos diría que no es responsabilidad de esta cámara y que lo único que tiene que hacer y que puede hacer es aprobarla después

es en mi opinión votar a favor de que el consejo vasco de finanzas traiga esta ley de aportaciones aunque el entramado institucional no nos guste y no nos gusta nada

todas esas reformas que nosotros hemos venido defendiendo pero en fin venir a decir lo que usted ha dicho votar en contra porque el partido popular

pues ciertamente un poco raro pero sí ustedes habían hablado ustedes habían pactado y esta respuesta del partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi responde al pacto que tienen ellos firmado solo así se entiende gracias

bai eskerrik asko mahaiburu andrea la verdad es que ha habido algunos de los argumentos que me han resultado sorprendentes sobre todo por la parte que los lanzaba no he acabado de entender del todo la posición del partido socialista en relación a un tema que creo que tiene

en otros parámetros más allá de mantener no sé qué

a mí me ha dado la sensación de que no quería decir si hay que cambiar o no hay que cambiar la ley pero bueno

el grupo técnico de trabajo lleva ya bastante tiempo trabajando sobre este tema

muy fuertes y usted sabe tan bien como yo pues que hay diputaciones que insistentemente a algunas de las modificaciones técnicas que se pueden plantear respecto a esta ley cada uno sabrá por qué pero si aquí queremos tener y preocuparnos del bienestar de todos

sistema bat mantentzeko modua no podemos encontrarnos que cada vez que hay un desajuste en la recaudación o por circunstancias

que tiene que empezar a yo te doy porque tú me quitas yo te quito porque yo te doy y llegamos a un acuerdo aquí entre cuatro partes

señor damborenea yo creo que a usted a veces que parece que tira de hemeroteca

de lo que ustedes dicen y de lo que ustedes hacen miren en el año dos mil siete

la ley actual que después ha sido prorrogada porque tenía una vigencia hasta el año dos mil once dijo que esta nueva ley garantizaba la estabilidad financiera

es decir consideró que era un buen acuerdo y la consideró una buena ley que tuvo que hacerlo bajo el planteamiento de la abstención

al margen de lo que estaban negociando como diputado general en el consejo vasco de finanzas con las otras dos diputaciones y con el gobierno vasco le impusieron que se fuera a la abstención con todo un rosario de declaraciones por parte

esto era el año dos mil siete ustedes han podido cambiar bueno veamos qué han hecho ustedes desde el dos mil once hasta el dos mil quince sabe en qué año vivimos

pues desde el dos mil once hasta el dos mil quince ustedes han compartido consejo vasco de finanzas con el partido nacionalista vasco y bildu ha compartido consejo vasco de finanzas con el partido nacionalista vasco los dos

no han tenido tiempo de proponer una ley de aportaciones nueva no han tenido tiempo desde

que sea el partido nacionalista vasco el que reúna a los responsables de las instituciones

hace unos cuantos días que hasta el dos mil diecisiete no tiene intención de mover un dedo aunque diga que lo está estudiando

con este escenario estamos aquí y usted viene y ya que esta mañana nos lleva diciendo a todos que no nos enteramos de nada parece que no se ha enterado

hasta el dos mil diecisiete de hacer absolutamente nada sin embargo usted quiere que haya una nueva ley de aportaciones

planteando una nueva ley de aportaciones fuera un fin en sí mismo fuera la panacea ya tenemos resuelto el mundo ya ha salido adelante la petición de una ley oiga no no el compromiso político exige mucho más el compromiso político exige que usted venga aquí y diga para qué quiere cambiar la ley de aportaciones yo ya le digo para qué quiere cambiar la ley de aportaciones no para qué quiere cambiar la ley

ya veremos si se cambia no se cambia cómo se cambia no usted quiere entrar en una guerra de territorios a consecuencia de la ley de aportaciones

diciendo que álava está con poca financiación volviendo a plantear el problema de más foralismo

que lo que tiene que haber es más país porque tiene que haber más ciudadanía y porque tiene que haber más igualdad y porque tiene que haber más derechos pero ustedes quieren entrar en esa política provincianista

muy de aquella formación política que proponía aquellas consideraciones políticas alavesistas

usted tiene que venir aquí y tiene que decir qué ley le gustaría en qué orientación y sí usted quiere hacer ese debate yo hago ese debate y si

proponemos luego al consejo vasco de finanzas proponemos al gobierno vasco y proponemos a las diputaciones forales que en base a una serie de criterios

como hicimos por cierto con la reforma fiscal que trajimos las propuestas políticas

hacer la normativa porque ya sabíamos quien tenía la competencia y la hicieron quienes las tuvieron que hacer

de profundidad serio responsable riguroso

la política y que se toma en serio el parlamento y usted

ni la política ni el parlamento y por eso ha traído esto que lo ha presentado diciendo yo aquí no traigo nada efectivamente usted en este momento es la nada

si como se solía decir progresa adecuadamente eskerrik asko

eskerrik asko berriro ere legebiltzarburu andrea señor prieto en el repaso de quien estaba

en el consejo vasco de finanzas se la ha olvidado decir que estaban ustedes también

en el que en su caso si tenía que haber una ley justo preparada para cuando terminara la vigencia inicialmente prevista los trabajos se tenían que haber hecho desde el dos mil once ustedes estaban allí como los demás

guztiok ditugula señor maneiro a usted el consejero lo que le dijo es que por encima de los colores están las instituciones

están las instituciones eso es lo que le dijo ha dicho que es falso lo que yo he afirmado que he afirmado que es necesaria tener resuelta

no he afirmado eso es más he insistido aunque no es un requisito imprescindible sí es el escenario mejor para poder abordar esta cuestión sobre la que estamos discutiendo

agertokirik zuzenena la legislatura anterior usted también se ha olvidado es que ustedes apoyaban al gobierno socialista cómo nos olvidamos porque claro dice en la legislatura anterior estaban los socialistas y ustedes apoyando también aquel gobierno alguna responsabilidad tendrán también porque en qué consistía el apoyo al gobierno

para terminar repasando una comisión de hacienda de las juntas generales de álava he encontrado un párrafo

juntero ramiro gonzález y le decía al entonces diputado general hablando en relación con la modificación de la ley de

de la ley de aportaciones habrá que hacerla o por lo menos intentarlo desde el consenso desde la seriedad y alejándola del debate partidista

señor de andrés porque esto la propuesta nos la dice usted hoy aquí pero nos lo dijo usted antes en una comparecencia pública en plena campaña electoral y eso no es manera